eta horretan jarraituko dugu entiendo que estamos

en servicio público de teleasistencia se ofrecen condiciones adecuadas

dispone de una calidad contrastada sirve de modelo de referencia a otras

es pionero en su dimensión socio sanitaria y lo más importante atiende razonablemente a las personas usuarias que se muestran

también hay que decir y estoy contigo que con la modulación que hay que hacer de la respuesta de una persona mayor con respecto a la plantilla que le preocupa

nos preocupa a todos y a mí también considero que garantiza las condiciones laborales de las personas que la integran

que desde la parte social hay reivindicaciones sobre las que no hay acuerdo con la empresa subcontratada hemos mediado para fijar servicios mínimos hemos mediado para evitar las jornadas de paro seguiremos midiendo para tratar de lograr un acuerdo entre la empresa y los trabajadores

trabajadores y trabajadoras del servicio de teleasistencia porque creemos que es un gran servicio creo que la calidad de servicio y su futuro están garantizados

y no creo tampoco que haya que adoptar medidas extraordinarias para corregir el rumbo del servicio la dinámica de mejora continua de los últimos años nos ha situado como modelo se presta un servicio de calidad las personas están satisfechas las personas trabajadoras desempeñan su labor con vocación

y creo que mediante la negociación que es el único instrumento que tenemos entre las manos de la autonomía de las partes se alcanzarán acuerdos que satisfagan a todos

muchas gracias presidenta buenos días señor consejero el día treinta de diciembre el gobierno vasco aprobó parcialmente la relación de puestos de trabajo de lanbide servicio vasco de empleo sin la perceptiva negociación colectiva a pesar del artículo treinta y siete punto dos a del estatuto del empleado público establece que cuando

a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contemplados en el apartado anterior procederá a la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este estatuto sobre esta cuestión

porque además la jurisprudencia más reciente de la que voy a entresacar la sentencia de dos de diciembre del dos mil diez del tribunal supremo en el que razona

las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario en las mesas de negociación la sentencia que va más allá

a la nulidad de pleno derecho de la rpt por afectar al derecho fundamental de la negociación colectiva y le voy a entresacar

a los sindicatos en el procedimiento de elaboración de la rpt en el que estos formularon alegaciones

en la que primaba la dimensión de la potestad auto organizativa sin embargo en el caso que se juzgaba no hubo auténtica negociación colectiva a través del instrumento idóneo cual es la mesa de negociación que permite entre otras cosas que los razonamientos de los representantes de los funcionarios puedan ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar la disposición recurrida por ello tratándose de un requisito relacionado con el ejercicio de un derecho fundamental su ausencia debe valorarse como equivalente a la omisión de un esencial trámite procedimental incardinable en el artículo sesenta y dos punto unoe de la ley treinta barra noventa y dos de procedimiento administrativo

que le apoyaron a usted en el episodio que precedió a su nombramiento los mismos sindicatos

en la relación de puestos de trabajo que se ha aprobado parcialmente y algunas pruebas hay de ello porque en el trámite de audiencia de quinientos veinticinco alegaciones solo se han tenido en cuenta veintitrés y solo una afectaba a la rpt

los puestos que van a ocupar etcétera mediante la aprobación de esta rpt parcial

se están consolidando adscripciones de puestos de responsables de área de lanbide sobre los que pesan sentencias que las declaran no ajustadas a derecho revocándolas y condenando

mediante la aprobación de esta rpt parcial se están consolidando como personal laboral fijo que antes del inicio de las actividades de lanbide tenía relación de personal laboral indefinido al final solo se hace la rpt

que son justamente las que menos servicio público prestan hay también una creciente preocupación que habría que desterrar sobre la eventual posibilidad mera hipótesis de que ciertas parcelas de lanbide

creo señor consejero que es una ocasión también para disipar dudas al respecto y desterrar esa hipótesis si es que fuera plausible

que no parece que el departamento que usted dirige estén teniendo tratamiento en la rpt y le voy a poner dos ejemplos el primero no existe

no es posible y no es aceptable es decir en las oficinas de lanbide debe de haber

otro ejemplo que le pongo el personal se queja de carecer de formación e información suficiente porque de hecho en no pocas ocasiones son los usuarios los que le están explicando al funcionario o al personal que atiende la ventanilla sobre líneas de ayuda

que se van estableciendo los sindicatos mencionados representan el cien por ciento de la mesa sectorial de la administración general del país vasco y todos ellos afirman que no ha habido negociación muchas reuniones sí pero negociación efectiva no

afirman también que se pretende acometer la subsiguiente cobertura de los puestos creados lo que ha indignado

evidentemente todo esto señor consejero va a traer unas repercusiones muy negativas sobre el servicio además nos están

todo el proceso o aquellos procesos que se hayan puesto en marcha en estas condiciones

ese riesgo cierto creemos señor consejero que conviene evitarlo a toda costa porque como usted sabrá para estas horas la génesis de lanbide está constituyendo

interminable y un servicio público de empleo requiere

las mejores condiciones para su funcionamiento de no ser así

en un momento dado su predecesor en el cargo de no encontrar una relación de puestos de trabajo que se pueda aprobar pacíficamente

señalaba el señor aburto que el plan estratégico de lanbide no tendría sentido no sería posible llevarlo a cabo la pregunta que le formulamos va acompañada de un ruego le planteo primero el ruego retiren ustedes esa rpt parcial que han aprobado

cuáles son los motivos por los que el gobierno aprobó sin la perceptiva negociación colectiva y parcialmente la relación de puestos de trabajo de lanbide eskerrik asko

señor itxaso he leído con detenimiento la justificación y el contenido de su interpelación así como el contenido de las diferentes comparecencias

de representantes del departamento y de lanbide tanto en este pleno como en comisión además de las diferentes respuestas por escrito

de todo ello solo puedo concluir dos cosas que usted que ha seguido desde muy cerca el devenir de lanbide durante esta legislatura sabe perfectamente la primera

que no es este departamento de empleo y políticas sociales el encargado de negociar la rpt

sino el departamento de administración pública y justicia en el seno de la mesa general de la administración vasca la segunda por lo que se me dice

y que usted lo sabe esta semana acabo de culminar yo un proceso de reuniones introductorias con patronal y sindicatos y aunque no fue objeto

algunas fuerzas sindicales mencionaron este tema de la rpt no entré en la materia pero sí obtuve una conclusión clara

haberla ha habido aunque soy consciente de que llegar a acuerdos y satisfacer demandas a veces contradictorias entre sí a veces entre los propios sindicatos no siempre es fácil en ocasiones es muy difícil

y lo que es imposible ni dios quiere como le he dicho si quiere detalles de cómo ha transcurrido el proceso negociador

no soy yo en mi condición de consejero de empleo y políticas sociales el más

solo a modo de resumen le diré que se han producido más de veinte reuniones formales de la mesa de negociación entre el departamento de administración pública y justicia

a las que hay que sumar sin duda muchos otros contactos informales a nosotros lo que sí nos compete es el diseño del modelo organizativo de lanbide

para hacer de lanbide una herramienta más eficaz en la gestión de recursos sociales

en la contratación en función de ese modelo organizativo se ha decidido aprobar la relación de puestos de trabajo en dos fases la primera a la que usted ha hecho mención

y le pongo por ejemplo la unidad de control interno además de las jefaturas

era y la estructura de la cadena de responsabilidad de lanbide por ahí se ha empezado con relación a la unidad de control la novedad más relevante ya está creada y estamos en proceso de selección de la jefatura

esperemos que esté plenamente operativa y digo esperemos porque naturalmente esto también depende de que puedan producirse paralizaciones en el proceso de asignación de plazas

y con todo su derecho trabajadores y trabajadoras afectadas

a demorarse la segunda fase afectará a los puestos que constituyen la estructura básica de cada oficina de lanbide es decir orientador orientadora técnico de empleo y formación técnico de administración general administrativo administrativa y auxiliar

clarificar simplificando la estructura de las oficinas y homogeneizarlas una oficina para ser eficaz tiene que contar como mínimo con uno o una responsable de la oficina un o una orientadora un o una técnico de empleo

un o una administrativa y un o una auxiliar esto supone que por ejemplo la oficina más pequeña que existe actualmente la de oyón

a partir de esa estructura mínima se han ido cuantificando las dotaciones de cada uno de esos puestos en base a un estudio técnico de cargas de trabajo y otros aspectos cualitativos de cada oficina queda para los próximos años un estudio más profundo de reestructuración de ámbitos geográficos y su dimensionamiento interno por ejemplo tendremos que revisar la existencia de dos oficinas de lanbide en basauri en lasarte

o las propias dotaciones en función de la experiencia que nos ofrezca la nueva organización que llevamos a cabo o las nuevas necesidades de nuestra sociedad en materia de empleo

segundo tenemos que crear las oficinas territoriales estas unidades de ámbito

en esta nueva organización y al proponer su creación estamos pensando en apoyar a las oficinas locales en cuanto a ser elementos cercanos

de los problemas en apoyar a las oficinas locales en lo picos de actividad que sobrepasen las posibilidades de las propias oficinas

por otras integrales e integradas en la organización tratamos de cementar la organización de ponerle bases hacer que sean coherentes las instrucciones generales con las necesidades locales recoger estas necesidades para generar criterios generales de actuación

velar por el cumplimiento en cada territorio histórico de los objetivos del organismo

tanto las sociales como las institucionales y solucionar las dificultades de relación existentes con las instituciones y entidades de ámbito de territorio histórico contaremos con una unidad que sistematizará estas relaciones en definitiva

aspiramos a crear un modelo de gestión de las ayudas y los programas aspiramos a impulsar la definición de nuestras propias políticas activas de empleo

en cuarto lugar tratamos de lograr un modelo integrado de formación para el empleo en euskadi apoyando también la formación profesional y en definitiva

eficiente para las personas y los ciudadanos vascos y un último apunte puesto que tiempo tengo sobre el personal de seguridad en las oficinas

pero se nos ha trasladado de vez en cuando que más de una vez en algunas ocasiones los propios trabajadores de lanbide se sienten

por algunas actitudes de ciudadanos que se pueden entender dada la presión a la que están sometidos en su propia situación pero que nosotros tenemos que proteger también
a nuestros trabajadores y trabajadoras eskerrik asko

señor consejero efectivamente que ha habido muchas reuniones de eso sí tenemos constancia y las centrales sindicales en ningún momento han negado ese hecho

lo que viene a decir en definitiva es que no basta ese tipo de reuniones hace falta imperativamente una mesa de negociación stricto sensu que eso es lo que no ha habido y los sindicatos es lo que

en los términos estrictos en los que se entiende una mesa de negociación que haya habido consultas que haya habido reuniones justamente esta sentencia que acredita una jurisprudencia ya reiterada lo que dice es que a falta de una negociación efectiva

nulo de pleno derecho una aprobación de esa naturaleza usted me ha dicho algo que también en su momento me señaló su predecesor y es el hecho de que efectivamente este asunto la rpt descansa sobre función pública y a ese argumento opuse en su día y opongo hoy

lanbide servicio vasco de empleo es un negociado de su responsabilidad que el servicio vasco de empleo es

es la médula de cualquier política activa de empleo que lanbide desde su primer momento hasta hoy está conociendo un iter plagado de dificultades plagado de inconveniencias

de desacuerdos que están haciendo inviable que están haciendo poco eficaz poco prestigiado el servicio de empleo yo no ignoro o no

va de suyo y efectivamente no tengo porque dudar de ellas pero lo cierto señor consejero es que este lunes

por el cien por ciento de los sindicatos que esto preludia un camino a seguir muy poco edificante que plantea incertidumbres muy importantes sobre la marcha del servicio que la judicialización de estos procesos

a empantanar una vez mas dejando el servicio y las expectativas que debiera de atesorar muy alejadas de una consecución inmediata yo le hablo

político no tanto técnico porque además me quedaría incluso un poco grande lo que le digo señor consejero esta es una responsabilidad que tiene usted como consejero y responsable del departamento el hecho de que esté en función pública obedece entre otras cosas a que lanbide también en su momento

se utilizó como un punching ball de ahí

que de alguna manera en su momento anunciábamos que traería problemas de esta naturaleza de falta de operatividad seguimos en ese empeño por aquello

un camino lleno de incertidumbres yo no le voy a plantear que deshagan el camino andado porque ya se que lo de la rectificación no está en el acerbo político pero lo que sí le digo es que ese camino está lleno de dificultades está lleno de escollos que en su momento anunciábamos y que los tiempos están demostrando que así son dejando a un lado esa cuestión

lo que sí le pedimos señor consejero es que retire esa rpt que trate de llegar a un acuerdo para hacer una única rpt que dé satisfacción

de alguna manera evite la judicialización del proceso en el futuro que permita que el plan estratégico se ponga en marcha cuanto antes y por lo tanto señor consejero esta interpelación

desembocar en una moción es decir nosotros plantearemos que lo que aquí ha habido no es una negociación en concordancia con lo que dicen los sindicatos pediremos

y esperamos que efectivamente haya sintonía con la parte social y puedan llegarse a acuerdos que permitan desatascar este asunto

itxaso jauna en estos momentos está culminado un proceso interno de reasignación de puestos de trabajo del personal se hizo

a partir de ahí se ha abierto un periodo para que cada trabajador y trabajadora exprese sus preferencias en cuanto a puesto y lugar a fecha de hoy le puedo decir que se va a poder satisfacer la inmensa mayoría de las solicitudes realizadas

negociación ha habido en los catorce meses que se ha dilatado el proceso de negociación y la tramitación administrativa se han introducido mejoras sobre la propuesta presentada unas a propuesta de la parte sindical

yo sé bien que los procesos negociadores no dejan satisfechos a todas las partes y le digo señor itxaso ayer mismo tuve la ocasión

de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de lanbide de escuchar directamente sus opiniones y reflexiones y también sus críticas a este proceso

y las conozco es la primera reunión que mantengo con la representación de trabajadores y trabajadoras de un colectivo concreto

en este caso lanbide porque sé muy bien lo que me ha dicho usted y es que lanbide

fundamental para las políticas de empleo y sociales de nuestro departamento pero para demostrarle que al menos en nuestra opinión negociación ha habido le diré que a la propuesta de ochocientos catorce puestos de la rpt de octubre

creo recordar que se empezó con quinientos y pico trabajadores este último incremento de dotaciones administrativas en oficinas territoriales como refuerzo a la tramitación de ámbito territorial

se disminuye el número de dotaciones de auxiliares a favor de dotaciones de administrativos de rango superior en segundo lugar en mayo de dos mil catorce se añaden dieciocho puestos más a la rpt de ochocientos cincuenta pasamos ya a ochocientos sesenta y ocho y se crea con ello la unidad de control interno

en tercer lugar en junio de dos mil catorce

una rpt de novecientos dieciocho transformando en estructurales cincuenta puestos que hasta entonces eran temporales contemplados en el programa de apoyo a lanbide y así mismo se crean también los puestos de administrativo a extinguir para veintiséis jefes de área

se mejora la propuesta de rpt incrementando en ciento dos el número de puestos aumentando el número de administrativos sobre el de auxiliares iniciales

en cuanto a los jefes de área y ordenanzas también los sindicatos piden que se retire la rpt ayer lo escuché

no fui a desconvocar la huelga del dos de enero ellos saben lo que hacen

en la defensa de lo que ellos creen sus legítimos intereses lo respetaremos nosotros creo que estamos haciendo la labor que debemos hacer que por supuesto

europeo la pobreza energética mata mata física y socialmente la pobreza energética es

o la temperatura necesaria para vivir sin pasar frio pero también implica no poder cubrir necesidades básicas como la alimentación las comunicaciones o la higiene no hablamos como alguno podría pensar únicamente de

o falta de comodidad sino que estamos ante un problema gravísimo de salud el número de vascos afectados por la pobreza energética se ha incrementado en los últimos años consecuencia obviamente de la crisis económicas

de determinadas decisiones tomadas por este gobierno y también lógicamente como consecuencia de los recortes sociales que se han producido según

y las instituciones y el gobierno vasco en concreto en nuestra opinión no están haciendo todo lo necesario para acabar con esta lacra hace exactamente un año y digo exactamente un año porque fue el veintisiete de febrero se aprobó iniciativa en este parlamento este parlamento instó al gobierno a que en el ejercicio de la capacidad de autogobierno estableciera las medidas que fueran necesarias para impedir

o el gas si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas en especial en las épocas de mayor demanda este mandato parlamentario se incumplió

contra esta lacra y qué piensa hacer también en el futuro y yo le quiero preguntar muy directamente si el gobierno vasco ante esta lacra ante este gravísimo problema se va a mantener

respondimos por escrito estamos trabajando para identificar y determinar un mecanismo más eficaz que el que hemos tenido hasta ahora

lo más rápido y sencillo para nosotros hubiese sido incorporar

dado que esas ayudas también están destinadas a cubrir necesidades básicas de mantenimiento del hogar pero no era esa la voluntad del grupo proponente de la enmienda

es el dirigir estas ayudas a otros colectivos que puedan quedar fuera de las ayudas de emergencia social señor maneiro pero que tienen problemas para pagar su factura de energía

no es tan sencillo como pueda pensar identificar esos colectivos

articular los procedimientos para prestar esas ayudas por eso

que estamos trabajando para dar una respuesta lo más adecuada y rápida posible eskerrik asko

sí gracias señor consejero el problema es que este gobierno dice que está trabajando

sin resolverse a día de hoy se ha solucionado el problema de la pobreza energética en euskadi no actuaciones ha tomado el gobierno vasco en los últimos tiempos para solucionar este problema creo que ninguna este es el problema este es el asunto y efectivamente se pactó una partida con una cuantía por cierto irrisoria

esa cuantía se incorpora a los presupuestos y resulta que el gobierno nos responde que a día de hoy está trabajando en definir y determinar el mecanismo más eficaz de reparto de esta partida entre los posibles beneficiarios

y no se sabe exactamente para qué se aprobó y cuál es su destino

sin saber para qué y mientras tanto hay ciudadanos vascos que están pasando frio en su casa esta es la realidad y yo ciertamente alucino

hay ciudadanos que están pasando frío que sufren pobreza energética y sin embargo hay una partida ahí cuyo destino se está estudiando a día de hoy dos meses después de que fuera aprobado yo lo que le pido

a estas injusticias yo le pido que ponga en marcha un plan de lucha contra la pobreza energética y evidentemente que atienda a todos los ciudadanos que padecen

las ayudas de emergencia social y rápidamente que se habilite

de acuerdo con usted señor maneiro hay ciudadanos que están pasando frio

tenemos encima de la mesa una proposición no de ley instándonos a que articulemos las ayudas a través de entidades del tercer sector

no nos parece mal pero eso requiere dar respuesta a algunas cuestiones que son complicadas quién establece los criterios a la hora de establecer prioridades

es importante porque en general estas entidades pueden tener puntos de vista diferentes

por eso trataremos de canalizarlo a través de ellas por otra parte para acceder a estas ayudas hay que excluir a quienes acceden a las ayudas de emergencia social

que la unidad de convivencia lleve constituida menos de una año tener menos de dieciocho años

y es aquí cuando nos vienen muchas preguntas a las que todavía estamos respondiendo sabemos con la urgencia con la que tenemos que responder porque dentro de poco va a ser primavera

a quién se dirige la ayuda a las personas o a las unidades de convivencia cuando comparten vivienda cómo controlamos la situación económica global de la vivienda

qué hacemos con las personas con derecho a ser perceptoras que se han quedado

por haberse agotado el presupuesto como ve

que llegue realmente a quien esté destinada y en igualdad de condiciones hay que tomar decisiones previas que requieren su tiempo

entre todos nosotros nos hacemos responsables de la tardanza

en tanto que podamos y lo que sí le aseguro es que en dos mil dieciséis aquellas personas que se dirijan a este gobierno

atendiendo a esta partida que también esto se ha aprobado no pasarán tanto frio como este año

egun on guztioi señor toña podemos decir que ha empezado cuestionado

sociales se ha planteado un debate sobre su continuidad en el cargo y en consecuencia

pero nada más lejos de la realidad cuando el lehendakari ya

su apoyo y su respaldo de forma inequívoca y ya por lo tanto tenía

como consejero de empleo y políticas sociales pero está claro que los ciudadanos vascos hemos asistido a un paripé a un doble paripé porque por un lado la decisión ya estaba tomada pero cuando el lehendakari ya tenía tomada se empeña en delegar la decisión en la comisión ética y digo un doble paripé por una parte por esta razón y por la otra razón

la propia comisión señala que no es competente para pronunciarse sobre dichos hechos porque es competente para pronunciarse sobre hechos acaecidos

del cargo en este caso del cargo de consejero pero viendo que va a seguir siendo consejero el consejero de empleo y políticas sociales sí queremos saber desde el grupo popular qué criterios va a seguir en su departamento al frente del departamento de un importante departamento para corregir la falta de resultados

queremos saber sus verdaderas intenciones para corregir el rumbo de este departamento euskadi presenta ritmos de creación de empleo inferiores a los de otras comunidades autónomas

la restructuración de lanbide el fracaso de la mesa de diálogo social con apenas varias reuniones en el último momento los déficits en lanbide

manifiestamente mejorables muy lejos de los resultados que se esperaba un dos por ciento y desde luego la mala gestión de las prestaciones sociales

necesidad inaplazable de tomar medidas efectivas para subsanar

estas deficiencias porque está claro que el consejero aburto emprendió una clara huida hacia delante cerrando los ojos ante la evidencia por eso le preguntamos qué criterios va a seguir usted para revertir y corregir el rumbo de su predecesor señor aburto al frente del departamento de empleo y políticas sociales

eskerrik asko mahaiburu andrea señora garrido no voy a entrar con su entrada sobre mi persona

en un escenario de extrema dificultad presupuestaria y con un número creciente de personas en situación de dificultad

el gasto en políticas sociales se han alcanzado acuerdos relevantes e importantes en el desarrollo de la ley de servicios sociales se han aprobado planes de empleo que han ayudado a

en el que nos encontrábamos sumidos mi propósito es seguir incidiendo en esta materia defensa del gasto social búsqueda de acuerdos

con agentes políticos e institucionales y sociales para fortalecer nuestro sistema de bienestar social y de compromiso con nuestros ciudadanos más desprotegidos
a quien nos debemos particularmente el departamento que dirijo eskerrik asko sailburu jauna

señor consejero nosotros el grupo popular nos ceñimos a los hechos

consejero en el desempeño de sus funciones pero mire en un escenario de crisis presupuestaria y de ajustes presupuestarios mejor dicho lo que tiene que tener un gobierno es claras las prioridades y este gobierno el gobierno del señor urkullu del que usted forma parte no tiene claras cuáles son sus prioridades

en el ejercicio de sus funciones ha tenido un mal comienzo con sus primeros anuncios

en las ayudas a las familias en las ayudas a la conciliación se da un nuevo tijeretazo porque la cantidad habilitada va a servir solo para cubrir

en un futuro no van a llegar para cubrir todas las solicitudes que se van a formular este año esto es algo que ya pronosticó el partido popular denunciamos la falta de voluntad de este gobierno

no los ampliaron por eso le hemos puesto la solución encima de la mesa de que se configuren como derecho subjetivo y aprobando esta propuesta ustedes tienen la posibilidad de rectificar esa decisión

que las partidas destinadas a la cobertura de rgi pgv y ayudas a familias por hijos e hijas han aumentado en función de la demanda porque es un imperativo legal porque son derechos objetivos las aes han crecido cada año

a la conciliación de las que estoy convencido que no habrá que suspender en el presente año y con respecto a lanbide aún recuerdo

algo habremos hecho lanbide no funciona aún como nos gustaría pero funciona señora garrido funciona

damos respuesta a la creciente demanda de servicios de la ciudadanía vasca que aumentado por las causas que todos conocemos damos respuesta porque su personal

que en todo caso merecen ser escuchadas realiza su trabajo con vocación de servicio a la ciudadanía atendiendo a sus demandas con rigor y con los medios de los que dispone y con independencia de qué gobierno sea el que dirija este departamento

mi empeño va a estar en mejorar esa realidad de lanbide el servicio que prestan a las personas en seguir promoviendo los acuerdos políticos institucionales y sociales

el mejor empleo decente posible empleo decente señora garrido en luchar porque nuestros jóvenes desempleados accedan al empleo y en que los empleos precarios

en la atención a las personas en situación de dificultad en seguir facilitando el acceso a una vivienda a personas que no tienen posibilidades de acceder a una vivienda digna

del empleo sean menores que en el conjunto del estado yo le digo pero es que también partimos de un menor nivel de paro empezamos más tarde con la crisis nos afectó más tarde porque

estaba mejor preparado eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor consejero

el otro día alguien me preguntaba que por qué le hacía a usted esta interpelación siendo el de hacienda y se le hago porque es el del dinero y el que lleva los presupuestos y el que

de modificar las partidas de los presupuestos yo le voy a recordar que nosotros hace tres meses cuando se debatió el presupuesto

en las parciales que el presupuesto para este año se incrementaba en más de cuatrocientos millónes de euros de los cuales ni uno solo de esos euros iban por ejemplo a fomentar la inversión

bueno hoy tenemos los datos del cierre del año dos mil catorce del año pasado de hace dos meses que confirma que la economía vasca evoluciona peor que la media española y que la recuperación económica aquí en el país vasco está siendo más lenta

y no perder mucho el tiempo pues si nos vamos a los datos del instituto vasco de estadística

en el país vasco el uno coma uno y este menor crecimiento evidentemente se ha traducido

y mientras en españa se ha reducido el paro en el dos mil catorce y prácticamente todas las comunidades autónomas han reducido el paro nosotros el país vasco somos la única que lo hemos incrementado en el año dos mil catorce y me da igual que usemos los datos de la epa

o que usemos los de los servicios públicos de empleo que nos decía el consejero

que ya no había colas en lanbide entonces uno la pregunta que se tiene que hacer es si ya nadie cree en lanbide a la hora de conseguir un empleo

y evidentemente habiendo cada vez más paro pues no parece que sea

pero bueno con los servicios de empleo evidentemente también se incrementa el paro es decir coinciden todas las cifras y en el país vasco

del catorce coma dos al dieciséis coma seis mientras que en españa bajaba del veinticuatro coma dos al veintitrés coma siete

nuestros datos se incorporan a los de españa es decir puestos ya

pero bueno son los que son y el efecto es simplemente comparativo como le decía

esas medidas de inversión que incentivaran la creación

en el país vasco posteriormente en el mes de enero el gobierno de españa puso sobre la mesa un instrumento una herramienta para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran refinanciar su deuda y el pago de sus intereses

por lo que leímos en la prensa porque suponía una pérdida de autonomía financiera

me pida perder autonomía financiera y me ofrezca

de momento nadie está dispuesto a quitarme esa autonomía financiera

que yo estoy dispuesto a perderla y aquí estamos hablando de que este gobierno como otros gobiernos autonómicos podrían haber dispuesto de decenas de millónes de euros que se podían dedicar

en función de las prioridades del gobierno por ejemplo a fomentar la inversión

la inversión porque este gobierno sí que plantea que el fomento de la inversión sirve para crear empleo

y por eso lleva este gobierno prácticamente un año y medio dos años reclamando que el gobierno de españa invierta en el país vasco la y la y la y cosa que se está haciendo por cierto

las líneas del metro y la inversión en el metro entonces parece que para el gobierno vasco la inversión real

y sí crea empleo y tira de las empresas y tira de la economía y frena el paro otra cosa es que eso que exige los demás no se lo aplica

le he citado esa fórmula que se acabó el plazo en enero para las que quisieran acogerse a ella y que este gobierno no se acogió una forma de obtener

gratis para poder fomentar el empleo bien no se hizo y digo que exigen a los demás

y no se aplican esas mismas medidas o doctrinas al propio gobierno

ayer mismo hubo un acto en el euskalduna en el que el vicepresidente de la comisión europea estaba presentando

en el que participaba el lehendakari y el lehendakari estaba

y que ya era hora que desde europa con lo cual estamos todos de acuerdo

y nosotros le tenemos que decir al señor lehendakari que también nos parece muy bien pero haber pero a ver cuando ellos se apuntan al carro no cuándo este gobierno se piensa

cuándo lo que dice a los demás que le parece bien y que tienen que hacer se lo aplica en algún momento

y entonces cuando ayer el señor lehendakari decía

que rememos todos juntos por el empleo pues nosotros lo que le tenemos que decir es que coja un remo y empiece a dar paladas con los demás porque así a lo mejor dejamos de ir a la cola

empezamos a crear empleo más rápido a lo mejor así empezamos a salir de la crisis porque yo quiero recordar que hace tres años lo que se planteaba es que teníamos que tener las condiciones para salir los primeros de la crisis y ahora empiezo a oírle a este gobierno y no solo por boca del anterior consejero

nuestra economía entramos más tarde en la crisis y salimos más tarde a lo mejor entramos más tarde en la crisis

se tomaron algunas medidas en el año dos mil nueve y que luego se dejaron de tomar y este gobierno tampoco las ha recuperado

y como no las ha recuperado seguimos como estamos

nosotros vamos creciendo como todos los españoles ahora claro en los sitios donde las demás administraciones colaboran más o cooperan más pues parece que les va algo mejor

los que estábamos allí y de los ciudadanos el paro era la primera prioridad en esta comunidad autónoma

nuestra interpelación era a ver si iban a seguir ustedes así como hasta ahora

mirando y exigiendo a los demás que hagan lo que ustedes no hacen

es decir yendo a remolque y diciéndonos el gobierno vasco que es que tenemos la tasa de paro más baja de españa

lo cual tampoco es merito de este también me podía haber dicho que tenemos la renta per capita más alta pero claro desde hace cien años

o sea que no me de datos que son obvios y conocidos y que no responden evidentemente a la actuación de ningún gobierno y menos a uno que lleve dos años o tres años o cuatro años

los datos trimestrales ya vi la nota que sacaron ustedes el otro día

yo le he dicho oiga de año a año el paro en el país vasco dos mil catorce ha subido ha subido medido en términos epa medido en términos servicios de empleo

somos la única comunidad en la que ha subido eso es lo que le he dicho desde el principio yo no le estoy diciendo que somos las que menos paro tenemos yo le he dicho

me habla usted claro es que tenemos una economía esto

que tampoco es ningún mérito de este gobierno ni de los anteriores gobiernos de estos verdad es decir es una región muy industrial en españa desde hace muchos años también

si quiere hablamos de eso porque claro entre la pérdida de empleo del año pasado básicamente se ha perdido empleo industrial el uno coma ocho por ciento de empleo industrial es lo que hemos perdido o sea que cuando encima estamos hablando que es el que da valor

en esta cámara que vale mucho más un puesto industrial que uno en el sector servicios

por todo lo que aporta bueno pues estamos perdiendo

esos puestos de trabajo en ese sector en el industrial y no le voy a hacer en comparativo de hace

el porcentaje en la economía vasca del sector industrial en cuánto estaba y en cuánto está ahora y cómo hemos ido bajando porque igual son diez puntos

me dice usted que no hablo de osakidetza ni de educación no he venido a hablar de empleo

y no me diga usted que es que con menos recursos hay que atender más gastos oiga como todas las administraciones a ver si el gobierno vasco es el único

se le ha reducido los ingresos y tiene el gobierno de españa evidentemente

como todos los gobiernos y la unión europea igual porque depende de la financiación de los estados y ninguno ha estado boyante salvo alemania algún año

ahora los demás se han ocupado de hacer algunos deberes y liberar fondos para que la inversión

no como antes evidentemente pero sí fomentando más la creación de empleo cosa que nosotros íbamos echándoselo en cara a este gobierno desde hace más de un año me decía usted no este año se incrementa la inversión en veintidós millónes

en el debate de presupuestos porque usted me estaba haciendo una trampa en el solitario usted me estaba comparando el presupuesto de dos mil catorce el que presentó a finales del dos mil trece con el real que había en septiembre de dos mil catorce y que usted nos presentaba para este año era inferior en veinte millónes en esa inversión

de los cuatrocientos millónes de euros de más para este año como usted mismo reconoció iban básicamente a pagar

y a partir de ahí usted me puede hablar de todos los planes los programas y todas las cosas que

este gobierno pero es evidente que ni un euro más fue a ninguno de ellos ni uno porque esta cuenta es muy fácil si disponemos de cuatrocientos millónes de euros más en qué nos lo hemos gastado en el pago de la deuda

y lo compare usted aquí está el crecimiento de la inversión por lo tanto

de su hilo argumental dos haga bien la cuenta porque la ha hecho mal

no hacen referencia a operaciones financieras es gasto para operaciones no financieras entiéndalo la financiación de las operaciones financieras

se lo digo porque sino usted no conoce exactamente y tendría una inconsistencia en su argumentación las operaciones financieras del endeudamiento de años anteriores no están vinculadas a las aportaciones y usted lo debe saber

están vinculadas a operaciones financieras que van en el presupuesto de este año tres

el gasto operativo de este año se reduce pero por algo que usted tiene que saber evidentemente porque es de conocimiento público

que supone que tenemos alrededor de doscientos millónes menos de gasto de ingreso financiero para gasto no financiero operativo

y que se sumitiga en una parte por un incremento de las aportaciones y usted tiene un

dedicado a la renta de garantía de ingresos y tiene treinta y dos millónes más para el gasto del departamento de educación

y tiene cincuenta millónes más porque hay que pagar una cuarta parte de una paga extra del año dos mil doce que está pendiente y que se va a pagar progresivamente

esas son las reglas del funcionamiento del gasto en las administraciones públicas se lo digo y por lo tanto como me remito a las páginas de los presupuestos

muchas gracias cuesta creerlo pero al parecer se ha iniciado recientemente una campaña denominada

con el que el gobierno vasco pretende animar a los euskaldunes a seguir hablando en euskera

haya personas que no entienden el euskera es decir justo lo que nos habían enseñado a por educación no hacer en la presentación de la campaña el viceconsejero de política lingüística consideró sin embargo que no es una falta de respeto seguir hablando en euskera cuando en el grupo de personas en el que uno esté hay gente que no lo entiende el viceconsejero puso

decía le décimos que no venga al que no sabe cocinar o le enseñamos cómo hacerlo por no saber jugar al futbol arrinconamos a alguien o le invitamos a jugar con nosotros en nuestra opinión comparar la actitud ante unas aficiones con lo que es la comunicación humana que se realiza fundamentalmente de forma oral

e inapropiado el señor bastarrika señaló que el objetivo de la campaña no es hablar en euskera a una persona que no entiende nada

y mostrar a la gente que poco a poco puede entenderlo tender la mano con respeto

muchas cuadrillas de amigos compañeras de trabajo o familias se romperían dejarían de comunicarse porque para qué queremos estar con personas con las que no queremos

en fin señora consejera le parece razonable esta campaña o más bien como a nosotros le parece un auténtico disparate dígame que

dígame que no ha fichado como asesor de política lingüística al señor isasi

porque si me detuviera a valorar los diversos descalificativos que ha vertido usted en su pregunta agotaría todo mi tiempo galdetzen duzu ea arrazoizkoa iruditzen zaigun kanpaina ba bai

sí señora consejera descalificativos no recuerdo haber utilizado

el impulso del euskera y su uso cómo explicarle

de guerra santa en una especie de guerra social de enfrentamiento entre familias cuadrillas amigos o conciudadanos eso no puede ser no puede basarse en eso vamos a ver una cosa es animar a la gente a practicar el euskera

a fomentar una actitud positiva y activa una cosa es eso y eso está bien pero otra cosa es proponer que se hable euskera incluso cuando hay personas en el grupo que no lo conocen y en concreto me refiero a esta propuesta concreta que está dentro de ese programa a esta propuesta concreta no a otras

que se anime a la gente a seguir hablando euskera cuando está en un grupo donde hay personas que no lo entiendes esto es en fin cómo

absurdo nos gobiernan extraterrestres o seres antisociales

el departamento de política lingüística no es que haya ficha al señor isasi sino que directamente ha incorporado en su sección a personas antisociales

que plantean este tipo de argumentos este tipo de propuestas al conjunto de la sociedad pero

que los euskaldunes son mucho más razonables que los que nos gobiernan desde ese departamento y los euskaldunes no van a hacer tal cosa no se va a hacer esto

tal medida es absurdo lo importante es la comunicación

y porque las lenguas están para comunicarse no para levantar barreras entre conciudadanos retiren por lo tanto

la campaña la campaña dice exactamente los videos colgados dicen exactamente

no hablen en castellano cuando estén con alguien que no sabe euskera ese es el núcleo de la cuestión lo demás son adornos para escurrir el bulto eso es lo que dice el video con toda claridad que lo vean los ciudadanos

aldatuko bagenu a qué se refiere cuando pide que cambiemos el chip

respecto al resto de la población herritarrak bi hizkuntza komunitateetan

quiere dividir en dos comunidades lingüísticas a esta sociedad con esta campaña el gobierno

tratando de condicionar su comportamiento en la relaciones

y da consejos excluyentes que suponen un tajo en las relaciones personales

a que muchas personas se alejen del euskera no es sociolingüística

que cuando un euskaldun se encuentre en un grupo con otro que no sabe euskera no hable con él eso dice

a negar evidencias el video está colgado en la web del gobierno en irekia por eso mi intervención hoy lo que pretende hacer es defender la libertad lingüística de cada persona y rechazar la segregación social que traería

pero también tratar de evitar el perjuicio para el euskera el rechazo que producirá la división lingüística que promueve esta campaña son ustedes responsables de estar actuando

el progreso lingüístico y de convivencia en esta sociedad desde el ochenta y dos es lo que están haciendo por lo tanto

consejera en unos de los vídeos se ve el juego de pelota

luego una conversación de amigos en la que se habla de los niños cómo van a hacer la conversación si le enseñan euskera es decir la cuestión no es la comunicación entre personas

es al que no sabe no pasar a comunicarse con él y la solución que dice el vídeo

las relaciones sociales se van a establecer porque los euskaldunes

no van a hablar con él de los asuntos cotidianos aunque sean amigos o familiares sino que lo que van a hacer es euskera y el otro se va a quedar allí esperando para aprender claro está usted segregando

hay suficientes muros en esta sociedad para que ustedes levanten uno más el muro lingüístico los socialistas no estamos por eso defendemos

sociedad porque su lengua sea una u otra que debe respetarse la opción lingüística de cada uno cualquiera que sea le debemos dar motivos para estar harto de su país y menos debiera hacer eso el gobierno

y retire esa campaña por favor incluso desde el punto de vista de la utilidad gaste dinero usted en la promoción del uso del euskera razonable e integradora y no tire el dinero en estas cosas que solo sirven como le digo

euskal hiztunak horrela nahi duenean lehen hitza euskaraz bota dezala se trata por tanto de que el vasco hablante opte cuando así lo desee porque la primera palabra sea en euskera entiéndalo

se trata de mostrar a los vasco hablantes por medio de simples sketch y con humor situaciones en las que nos encontramos a diario e invitarle a la reflexión y a un cambio de chip igual usted no lo ha vivido pero muchos vasco hablantes así lo hemos vivido hablar en euskera no es falta de respeto como no lo es hablar en castellano nosotros no le

pero identificamos una situación en la que es muy corriente muy habitual que si hay alguien en el grupo que no sabe euskera automáticamente sistemáticamente

vemos que esas situaciones entre cero y cien es perfectamente posible encontrar también porcentajes distintos al cero y no que automáticamente si una persona tiene dificultades para hablar en euskera

si en un contexto hay personas que entienden euskera si tienen dificultades para hablar en euskera

porque las personas que tienen delante entienden euskera y se producirán situaciones en las que se darán estas conversaciones asimétricas

pero otro no habla el otro entiende y además lo habla y la comunicación entre los interlocutores

lo siento no compartimos su idea eskerrik asko

gracias señora presidenta el terrorismo yihadista que como todo terrorismo intenta imponer su proyecto totalitario se ha convertido en una grave amenaza para el conjunto de las sociedades occidentales los atentados de parís las decapitaciones

estamos ante un fenómeno terrorista diferente específico

operandi también distinto y que por lo tanto su forma de abordarlo prevenirlo y combatirlo también debe serlo

lobos solitarios euskadi no es ajeno a esta amenaza en agosto

operativas que extremasen la seguridad en esa fecha también un joven de origen árabe

y policías locales a los que estaba siguiendo es evidente por tanto que estamos ante una amenaza real y por lo tanto no podemos mirar

de prevenirlos con el objetivo de garantizar la seguridad pública por todo ello señora consejera le pregunto qué medidas piensa adoptar para que la ertzantza pueda garantizar

al igual que la policía francesa los mossos o la policía nacional

está ocupada en el seguimiento y en análisis del terrorismo

hoy no hay policía ni servicio de inteligencia que no lo esté es una de las preocupaciones máximas de seguridad una de las preocupaciones también más extendida más compartida y más trabajada isiltasuna mesedez gracias señora presidenta

en estos años se han desarrollado un importante marco normativo a nivel europeo y también a nivel nacional

los pilares de la persecución y de la respuesta de los actos delictivos dentro de esta estrategia con relación a la amenaza del terrorismo yihadista

el resto de las policías de su entorno acude a las mesas de trabajo que es convocada por el ministerio de interior y también hemos intensificado los flujos de información en colaboración con el centro de coordinación policial de hendaya esto es lo que nos corresponde hacer ahora es la única manera de lograr una eficacia real ante amenazas terroristas globalizadas de este tipo aunque también usted sabe señora llanos que no siempre es posible evitar que

señora consejera como usted ha dicho y como he dicho yo efectivamente euskadi no es ajeno a esta realidad y yo no pongo en duda que se lleve trabajando desde hace tiempo pero después de los atentados de parís el ministerio de interior decretó para toda españa el nivel tres por ello

a controlar infraestructuras críticas que puedan ser objeto de ataque terrorista sin embargo la forma de hacer esa protección

sindicales incluso su propia preparación formación e información

ha sido cuestionado en primer lugar que no se aplique de manera estricta la instrucción cincuenta y tres que recoge el catálogo de medidas de autoprotección de los ertzainas ante ataques terroristas

como le digo tras los atentados de parís se decretó la amenaza de nivel tres desde el departamento de seguridad no se han adoptado

nivel que exige que se haga la protección a través de la movilización de unidades especiales de intervención y de grupos especializados de los cuerpos

a proteger los puntos que yo le he mencionado y en el caso de la ertzaintza han sido

sin recibir formación suficiente a juicio de ellos

ciudadanía porque como le digo piden la aplicación estricta

la que protege a agentes como por ejemplo la que murió cuando estaba controlando el tráfico en paris y sin embargo aquí no se permite la aplicación estricta de esa instrucción señalan los agentes que las vigilancias han sido ineficaces y que el material utilizado ha sido insuficiente

de estas naturalezas no se han adoptado por tanto las medidas necesarias y por lo tanto es necesario que se hagan que se lo tomen en serio cuestión que creo que todavía no han hecho o señora consejera va a ocurrir aquí como en tolosa donde a entender a lo manifestado por los agentes no les dio el más mínimo apoyo

va usted señora consejera a considerar que la presencia de agentes especializados de grupos especiales genera tensión y que por lo tanto es mejor que estén pero que que estén o una vez más señora consejera la imagen va a primar sobre la seguridad
de la ciudadanía en general y de los agentes en particular eskerrik asko

hoy una de las preocupaciones de seguridad más extendida compartida y trabajada en el mundo también en euskadi mezclar a río revuelto los riesgos de la amenaza yihadista con reivindicaciones

sean desde luego no es propio de su responsabilidad política como ya le he indicado antes

en consonancia con el marco normativo europeo en el marco de los objetivos fijados por la unión europea el departamento de

hemos adoptado la graduación de los niveles de riesgo con criterios comparables

desde la oficina central de inteligencia se está efectuando

de los riesgos específicos en euskadi y desde esta misma oficina la oficina central de inteligencia se están desarrollando cursos formativos para el conjunto de los mandos de la ertzaintza y también de policías locales de transmisión hacia el conjunto de nuestras policías se efectúan análisis permanentes insisto permanentes en relación con las infraestructuras críticas

además con otros lugares que bien por su simbolismo o porque son lugares que tienen una cierta importancia o por lugares donde la concurrencia de personas

de los terroristas y evidentemente ya se han establecido medidas específicas

específicas adaptadas a cada uno de estos casos tanto para la protección de las infraestructuras como la protección de las personas y también por supuesto para la protección de los y las ertzainas que tienen que llevar a cabo estas tácticas preventivas y de protección

trataremos como le he dicho antes siempre de anteponernos a cualquier intento de creación de células terroristas en euskadi y evidentemente ante la intención
que puedan tener de provocar o de cometer algún tipo de atentado eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

nator la gestión pública también la del sistema sanitario público vasco debe regirse por criterios de calidad y de eficiencia

y además es una exigencia de los ciudadanos y ciudadanas los recursos

gestionamos el dinero de los impuestos quien gestiona el sistema sanitario es el gobierno y es a quien se lo han encargado los ciudadanos

en respuesta a múltiples de preguntas solicitudes de información incluso

de la comisión de salud al pac de durango creo que conocen que la actual dotación de personal garantiza una atención sanitaria de calidad

no obstante y ante la situación de descontento no de todos sino de algunos trabajadores del pac que como usted sabe ya existía cuando llegamos al gobierno en diciembre del dos mil doce desde osakidetza se han puesto en marcha numerosas acciones se han cambiado los responsables inmediatos pasando este centro a estar a cargo

se ha remodelado parcialmente el centro dotándole de más espacio se ha renovado su mobiliario y dotación tecnológica

con el apoyo de la urgencia hospitalaria del hospital de galdakao usansolo se ha realizado desde el servicio de prevención y seguridad del trabajo de osakidetza

pendiente de presentación en la comisión de salud y se ha adoptado al pac de la posibilidad de activar y disponer

una enfermera de refuerzo cuando es necesario y créame ninguno de los pac está a turnos trabajan por días hauek dira

en el pac de durango como usted conoce se han puesto muchísimas medidas como usted ha reconocido el pac de durango tiene la misma dotación

porque haya una o dos personas empeñadas que necesitan más por ese criterio pues entonces tendríamos

precise mire a quien le han encargado los ciudadanos que gestione el sistema sanitario es a nuestro grupo

se lo repito la actividad del pac de durango no ha aumentado sus recursos son proporcionales

y están ajustados a las necesidades de su demanda ustedes han tomado

pero realmente pongamos lo que pongamos el descontento es otro tienen una segunda enfermera de refuerzo eskerrik asko

lopez de ocariz andrea zurea da hitza gracias señora presidenta señora consejera señor consejero señorías

referente a la modificación no sustancial de las directrices de ordenación del territorio esta cámara el siete de febrero del dos mil trece aprobó una enmienda entre el grupo nacionalistas vascos y eh bildu

primero suspender el procedimiento de modificación no sustancial en las directrices de ordenación del territorio iniciado en el año dos mil diez segundo revisar las directrices de ordenación del territorio teniendo en cuenta una serie de retos sociales económicos medio ambientales mediante

que el grupo nacionalistas vascos llevaba en su programa de gobierno la revisión de las directrices de ordenación del territorio pues muy bien señora consejera

que le lleva a la consejería hace todo lo contrario arrincona la revisión de las directrices de ordenación del territorio no lo va a hacer no le interesa y retoma la modificación no sustancial iniciada por el anterior gobierno para reducir la cuantificación residencial y además con urgencia una urgencia de modificación

no hay demanda señora consejera creo que debemos de trabajar en la revisión de las directrices de ordenación que incorporemos este trabajo que usted se lo ha encontrado iniciado que se haga un documento de revisión y que hagamos un trámite ordenado como establece la ley

esta urgencia señora consejera sería interesante que aporte argumentos sólidos quiero recordarle señora consejera que esta cuantificación residencial es vinculante de las poquitas cosas vinculantes que tienen las directrices

es una de ellas y señora consejera se permite el lujo de calificarla de modificación no sustancial además señora consejera de

al margen de los procedimientos que establece la ley de ordenación del territorio así informó en comisión el resto sí seguirá los procedimientos de la ley no además sin el correspondiente procedimiento ambiental estratégico la señora consejera

no podía ser de otra manera no esperábamos otra cosa sería estupendo señora consejera que pase esta hojita modelo a tantos y tantos particulares empresas

tramitar expedientes en medio ambiente en la autoridad ambiental y que desde luego sufren verdaderas aventuras para conseguir un informe en tiempo razonable autoridad ambiental a que este pequeño

pasa desapercibido señora consejera además de hacer una modificación

modificación no sustancial cuando es vinculante con urgencias sin justificar sin el correspondiente procedimiento de procedimiento ambiental estratégico al margen de los procedimientos que establece la ley de ordenación del territorio sin amplio proceso de participación ciudadana como le pedían en esta cámara la proposición no

que es el trámite legal lo hace usted sin consenso de la comisión de ordenación del territorio del país vasco donde están representadas todas las administraciones competentes

hace una propuesta inicial donde solo se habla de rebajar el número de viviendas en los municipios así lo comunican las diputaciones y a algunos ayuntamientos sin embargo el informe que se

que se votó el dieciocho de febrero nada tiene que ver con el informe inicial informe segundo que no da lugar a hacer enmiendas

el dieciocho de febrero el mismo día de la votación del segundo informe francamente

este documento que presentan presenta

ser expuesto al público que se hubiera podido presentar alegaciones pero no todo es muy urgente la señora consejera tiene prisa

las votaciones a este documento fueron la diputación foral de gipuzkoa en contra la diputación foral de álava en contra la diputación

una abstención del pnv señora consejera es un no como una casa la votación de eudel abstención la votación de eudel abstención es un no triplicado por lo tanto señora consejera usted aprobó esto solo con los votos del gobierno solo con los votos del gobierno

un documento totalmente alejado del consenso hecho que es casi insólito en el órgano que generalmente toma los acuerdos por consenso

establece nuevas normas respecto a la clasificación del suelo modificación del planeamiento no solo habla de cuantificación residencial porque señora consejera que dijo usted en septiembre en esta cámara reparto competencial evidentemente las directrices de ordenación del territorio en particular en el tema de la cuantificación residencial marcan máximos solo máximos

lo que quieran las administraciones locales son administraciones mayores de edad a la que nosotros respetamos profundamente su capacidad de maniobra es amplia pueden hacer lo que quieran usted los respeta mucho pero luego les roba la cartera señora consejera porque el artículo ocho punto dos dice

se podrá concepto jurídico indeterminado que se podrá en función del consejero en función del propietario en función del alcalde en función de qué se podrá

si usted califica un suelo urbanizable en rústico

quién va a responder usted el ayuntamiento o la diputación quien responde no tenemos respuesta no sabemos

dice no se admitirán nuevas reclasificaciones de suelo no urbanizable a suelo urbano

a los ayuntamientos para hacer el modelo territorial de su municipio y además contradice la ley del suelo los artículos ciento tres y ciento cinco que da respuesta y que dice que son los ayuntamientos los competentes para hacer esto

prohíbe con carácter general las modificaciones de planeamiento que representa un incremento de capacidad residencial si no son renovación o redosificación esta prohibición

porque deja con las manos atadas y sin la competencia que la ley del suelo reconoce a los municipios para poder acometer modificaciones de planeamiento señora consejera usted presenta una modificación que no es revisión como le ha pedido esta cámara una modificación no sustancial cuando es vinculante

unas notas le han servido al margen de los procedimientos que establece la ley de ordenación sin amplio proceso de participación sin consenso de la copu usurpando competencias a los ayuntamientos y a las diputaciones

contradiciendo sus propias palabras en esta cámara sin un informe jurídico que avale el rigor del documento señora consejera

porque ante la falta de consenso tenía que haber dejado el tema encima de la mesa para su estudio y posterior revisión o análisis en lugar de esto aprobó el informe y continua con la tramitación aquí no pasa nada todo para adelante es muy grave que la ordenación del territorio

dónde está el respeto que decía usted tener dónde está el respeto señora consejera tiene usted intención de hacer una revisión de las directrices
de ordenación del territorio tal y como indica la ley de ordenación y respetando las competencias de diputaciones y ayuntamientos eskerrik asko

señora lópez de ocariz porque ha dicho usted una

y casi todas no ciertas por no emplear otra palabra en cualquier caso sí que tengo que decirle que me alegro que después de un año de estar trabajando este documento usted lo haya leído

he tenido ocasión de ver en primer lugar tengo que expresarle mi estupor ante la acusación a todas luces infundada

sin competencias en materia urbanística que han venido ejerciendo etcétera eso lo explico ateniéndome al texto de su interpelación

no sino que nos encontramos ante una modificación puntual en lo relativo a la cuantificación residencial efectivamente el anterior ejecutivo tomó la decisión en octubre del dos mil diez de iniciar un proceso de modificación

estaba incluido también este capítulo estaba incluido y además tengo que decirle aquí

al ejecutivo anterior los trabajos de diagnóstico de evaluación y de inicio de la revisión de las directrices habían iniciado su camino en el año dos mil seis por lo tanto

mucho tiempo este gobierno el actual

integral y completa el cuatro de marzo de dos mil catorce el consejo de gobierno

salvo para la cuestión de la cuantificación residencial por entender necesario y oportuno disponer de una fórmula mejorada y actualizada que facilite un cálculo

y de la forma que tienen nuestras ciudades y es precisamente de eso de una fórmula matemática de cómo se introducen los datos en una fórmula matemática

no hablamos de competencias señora lópez de ocariz no hablamos de competencias no de cambios de competencias desde luego le avanzo también para su tranquilidad que estamos trabajando en el proceso de la revisión de las dot en base en unos procesos participativos porque queremos que el proceso de las dot de la revisión completa de las dot

participativo y es algo que es realmente complejo y difícil de articular en eso estamos trabajando y verá usted sus frutos espero después del verano

es rotundamente falso que se diera un mes de plazo para presentar alegaciones fueron tres los meses para poder presentar alegaciones pero no

sino que la propuesta se había presentado anteriormente dos veces en la comisión de ordenación del territorio del país vasco en marzo y en mayo del dos mil catorce antes de empezar los procesos formales se había dado cuenta la comisión de ordenación del territorio a todos los agentes y tengo que decirle que a todos les parecía bien a todos les parecía bien y nadie

los temas de competencia estábamos hablando de una fórmula matemática todos estábamos de acuerdo de que estábamos hablando de una fórmula matemática precisamente con el objeto de comenzar y contestar de forma personal y directa las alegaciones realizadas a instancias de nuestro departamento y en particular la viceconsejería de planificación territorial mantuvo cuatro reuniones una con cada una de las tres diputaciones otra con eudel entre el once de diciembre y el nueve de enero

las respuestas a esas alegaciones escritas se enviaron a las personas alegantes el trece de febrero de este año

se remite formalmente a los miembros de la comisión entre otros diputaciones forales y eudel una propuesta de decreto para que sea informado

de dieciocho de febrero previamente a su aprobación provisional el informe previo a su aprobación provisional tengo que decirle que esta propuesta de decreto

sobre el que se realizaron las alegaciones en cuanto a la votación en la comisión también

importantes la diputación foral de gipuzkoa votó en contra precisamente por considerar que si bien esta propuesta supone un avance no es suficiente debería de haber ido más allá en la forma de computar cosas como las viviendas vacías los coeficientes de esponjamiento etcétera le invito

facilitar de la intervención muy oportuna y acertada del diputado de gipuzkoa del diputado errazkin la diputación foral de bizkaia no mostró objeción alguna a la propuesta pero se abstuvo

así nos lo dijo la diputación foral de álava tampoco nos dijo nada de competencias ni de este tipo de problemas que usted

eudel se abstuvo y aceptó nuestra propuesta de seguir reuniéndonos y trabajando juntos es más en eso estamos pero tengo que decirle además que hay más miembros en la

que votó a favor en la aprobación inicial

provisional previo a la aprobación provisional pero es que en el informe previo a la aprobación inicial la única abstención registrada fue la de gipuzkoa

todos los demás miembros votaron a favor todos todos los demás miembros votaron a favor y le estoy hablando de hace ya muchos muchos muchos meses casi casi un año

quiero insistir en que la propuesta de la cuantificación residencial es una propuesta racional que pretende adecuar una fórmula de cálculo de las previsiones de creación de vivienda nueva teniendo en cuenta o de acuerdo a la evolución de la población en los últimos años la variación del tamaño familiar

existentes en los municipios se trata más de asumir criterios de sostenibilidad y de responsabilidad sin ocupar o artificializar innecesariamente más suelo que el preciso que creo que es un discurso al que todos nos solemos sumar

en cuanto a la tramitación por supuesto está dentro de la ley

mis palabras en esta cámara porque evidentemente sigo

en su literalidad y creo que han sido muy oportunas y

las haya repetido por lo tanto en ningún caso

para la aprobación del planeamiento municipal esto sería imposible además

que un decreto no puede modificar una ley y cuando estamos hablando

hablamos de aquellas cosas reguladas por la ley del suelo por la ley de ordenación del territorio y nosotros estamos trabajando en un decreto que en ningún caso iba a modificar nada de lo recogido en esas leyes por terminar esta primera intervención estamos modificando una

establecida en el año mil novecientos noventa y siete y adecuándola a las necesidades de la sociedad y de los tejidos urbanos
que tenemos en el año dos mil quince eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

señora consejera he leído más cosas suyas y hablando de consenso usted en febrero de dos mil once

usted ante un asunto de una recalificación urbanística

de trece de marzo de dos mil nueve reunión en la que los miembros del pnv votaban a favor de esta recalificación y los de ea entre los que estaba usted votaron en contra pero eran minoría y se dio por aprobada la recalificación usted

que en su trayectoria en el ejecutivo nunca había visto un proceder similar

se aprobaban por unanimidad y en caso de no existir se aplazaban las deliberaciones a próximas citas para intentar alcanzar un consenso qué mutación ha sufrido usted se ha contagiado de aquello que denunciaba

rigor pero es que también he leído más cosas de lo que dice por ejemplo su directora de planificación territorial que lo decía hace pocos días antes del dieciocho de febrero decía el gobierno vasco quiere

o residenciales y darles un nuevo uso aumentando su ciclo de vida y esta es la base y el objetivo de la modificación de las directrices de ordenación del territorio que la semana próxima serán aprobadas provisionalmente

y qué quiere el gobierno lo dice su directora gestionar el suelo

eso es no nos venda a aquí motos porque eso es lo que se dice en los artículos y usted en los artículos en la propuesta documento el segundo documento que nada tiene que ver con el primero porque incorpora aspectos que no estaban en el primero sí señora consejera

o no ha visto usted el primer documento porque igual no lo ha visto no lo sé

sea sincera aténgase a la fórmula porque evidentemente todos podemos estar de acuerdo en reducir la capacidad residencial

y si hay cosas que están reguladas en la ley del suelo qué hace usted citándolas aquí en un artículo qué hace usted si ya esta regulado

tantas y tan seguidas yo le pido respeto respeto a las instituciones a las personas representan a las instituciones también respeto y que por favor reconsidere esta actitud retome la revisión no retome inicie la revisión que no que las ha dejado aparcadas

ni lo más mínimo por eso ha cogido esto no por casualidad porque le interesa esto no lo otro

a la revisión por qué no lo hace así cuál es el interés que tiene usted por qué esta urgencia y esta prisa explíquelo

ordenación del territorio las directrices de ordenación del territorio que iniciaron su revisión como hemos dicho

planteaban una revisión de esta fórmula nosotros hemos seguido con ese trabajo porque creemos que es necesario establecer una fórmula diferente se lo he dicho antes la misma fórmula mejor dicho pero con una incorporación de datos diferente

ordenación del territorio y hablábamos de cuantificación de viviendas resulta que en cada vivienda vivían cinco personas de media y en este momento

un tamaño medio familiar que puede rondar los dos coma dos o dependiendo de los municipios por poner solo un ejemplo de las variaciones que ha sufrido nuestra sociedad

nuestra forma de habitar nuestra forma de utilizar las ciudades en estos años que han pasado desde el cercano mil novecientos noventa y siete hasta hoy dos mil quince por eso creemos que es hora de poner en marcha una fórmula que se mida de una manera pero estamos trabajando en esa fórmula no en nada más no en todas esas cuestiones que usted se inventa y que usted nos cuenta que pretendemos hacer el texto del decreto de la aprobación provisional es se lo he dicho plantea grado de obligación y los mismos contenidos que el anterior que se presentó y que recabó todos los votos a favor excepto

porque todos entendíamos que era necesario hacer esa modificación de la fórmula matemática que establece el número de viviendas que

dice que compete al gobierno vasco dentro con los informes que debe de hacer dentro de la comisión de ordenación del territorio

urgencia no no va por procedimiento de urgencia le he contado que los primeros trámites fueron hace un año no va por procedimiento de urgencia lo que sí creemos que es necesario hacer la reformulación de esa fórmula matemática por lo que le vengo explicando todo el rato porque tenemos una sociedad y una demografía diferente queremos que las ciudades nuestras ciudades y nuestros pueblos crezcan urbanizando el campo creo que no creo que nadie en esta cámara quiere eso creo que ninguna administración quiere eso creo que todos nos hemos manifestado en ese sentido

tendremos que dotarnos de las herramientas que permitan que eso no ocurra porque si no seguiremos urbanizando el campo y por poner

por ejemplo el ayuntamiento de vitoria el ayuntamiento del municipio de vitoria quien por cierto tengo que decir que hizo una valoración positiva

pero aprovechó para hacer una valoración positiva además

acuerdo de concertación que había tenido con mi consejería con mi departamento

por ejemplo y qué pasa que si seguimos aplicando la fórmula que tenemos en vigor pues vitoria

en un parque de viviendas que estamos hablando de noventa y siete mil viviendas que tiene el parque de viviendas de vitoria

esta fórmula mejorada actualizada real con los pies en el suelo marca veintiséis mil de eso estamos hablando señora lópez de ocariz

de hacer las cuentas de tal manera que nuestros municipios sean más sostenibles más lógicos permitan una gestión mejor pero no de meternos en las competencias ni en casa de nadie pero a nosotros nos corresponde poner ese marco porque ese es el marco de la ordenación del territorio marcada en la ley de ordenación del territorio del año mil novecientos noventa y cuatro

insisto en ningún caso estamos metiéndonos en las competencias de nadie estamos modificando una fórmula matemática

por todo ello el parlamento vasco expresa su apoyo a todas las personas afectadas

en el día mundial de las enfermedades raras y se implica para lograr los objetivos planteados a través de las diez propuestas para este año dos mil quince manteniendo la protección de los derechos sanitarios y sociales de las personas afectadas

poco frecuente es fundamental seguir garantizando el acceso en equidad a los medicamentos y a productos sanitarios de uso vital para las enfermedades raras la identificación de pacientes a través del registro de enfermedades raras facilitar el acceso y la atención integral tanto a los pacientes pediátricos adultos y fomentar la mejora en el acceso a prestaciones y servicios

cartera común básica del sistema nacional sanitario facilitando la derivación autorizada por inspección a todas las personas afectadas por enfermedades raras